de salud y consumo en este periodo de sesiones tuvimos la oportunidad

satse en la que se nos habló de los riesgos psicosociales de las agresiones al personal sanitario y la preocupación que esta cuestión

en concreto se plantearon algunas cuestiones puntuales se hicieron referencia a algunas cuestiones concretas se habló del registro de agresiones y se nos dijo que las agresiones en el ámbito sanitario es el riesgo laboral que menos se declara por las dificultades que conlleva el interponer

los registros en el tema concreto de las agresiones al personal sanitario no recogen una foto real de las agresiones a este personal en relación al observatorio la comisión técnica de seguimiento de agresiones también se nos señaló que fue constituida en el año dos mil ocho pero que nunca se había reunido

se nos decía también que se daba una atención insuficiente la atención insuficiente que se presta a la persona

agredida y que en ese sentido las personas agredidas se encuentran desprotegidas y que en muchas ocasiones también sufren

acarrear o derivarse de la propia agresión física sino también secuelas en el ámbito

en el asesoramiento jurídico se hizo referencia también a una guía desconocida en el personal sanitario que en ocasiones el personal agredido se sentía agredido porque el protocolo

o la atención necesaria y suficiente una vez que habían sufrido una agresión y que no existían foros específicos de participación en cuanto a la formación también se nos decía que era la asignatura pendiente

de la prevención de la violencia del hospital el hospital de cruces pero que también llevaba esta comisión tres años

que no existía un plano no existe mejor dicho un plan de prevención específico

en marcha de prevención específicos en relación a esta cuestión en referencia a las campañas informativas se nos decía que los carteles

consultas en muchas dependencias sanitarias todavía se pueden ver esos carteles colgados de hace diez años en cuanto a las medidas de seguridad

desconocido por lo tanto muchas medidas que

y una revisión implantar nuevas medidas y otras cuestiones que se podían

en su momento pero que no estaban en funcionamiento en estos

yo creo que lo importante cuando hablamos de reducir las agresiones en el ámbito sanitario paliar sus efectos es hablar de medidas concretas en ámbitos también concretos como en el apoyo psicológico

la seguridad la formación la información la prevención y la investigación también de lo que pueda haber detrás de cada agresión concreta también en el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad esta cuestión ha pasado a ser una cuestión prioritaria

en el ministerio que ha elaborado recientemente un informe con recomendaciones y propuestas concretas ante esta problemática

en donde ya se da un enfoque integral y participativo se habla claramente de la cultura de la tolerancia cero se habla del fomento de políticas y planes concretos se habla de identificación de puntos críticos también con la elaboración de mapas de riesgos

y se habla de medidas formativas e informativas nosotros presentamos una interpelación al consejero una vez sustanciada

y consumo como he señalado al principio de mi intervención formulábamos decía una interpelación al consejero de salud con el propósito de conocer

si era propósito del departamento incrementar las medidas en relación

trabaja en la sanidad pública vasca con el objetivo de reducir las agresiones paliar sus efectos y prevenir también futuras agresiones

se comprometió de alguna forma a trabajar sobre este tema y

para evitar circunstancias violentas posteriormente también tuvimos la comparecencia del director

de forma también exhaustiva en la comisión yo lo que quiero decir es que esta claro que es una cuestión que es prioritaria que

para este gobierno y sobre todo es una cuestión en la que no se puede bajar la guardia creo que también como se ha dicho aquí

así también lo reconoció el sindicato de enfermería satse pero que sí es cierto que haciendo una lectura comparativa entre las medidas que se han impulsado entre todas las comunidades autónomas en otras comunidades en ciertos aspectos han podido avanzar más y se han puesto por delante yo quisiera también para finalizar esta intervención y antes de dar lectura al acuerdo que hemos acordado entre

la comisión de sanidad sí quisiera también poner el valor la labor que realiza los profesionales de osakidetza

vasca en sus distintos ámbitos porque yo creo que es una profesión muy vocacional que tiene un contacto muy directo con los usuarios con los pacientes y

en testimonios concretos en la comisión de sanidad

con referencia a las comparecencias que he mencionado pues a veces expuestos a poder sufrir algún tipo de agresión

no se puede generalizar pero lo cierto es que es una realidad que esta ahí que no podemos obviar y que hay que seguir atendiéndola y tomando medidas en los distintos ámbitos concretos a los que me he referido hemos alcanzado una enmienda de transacción que vamos a apoyar todos los grupos en principio por lo que se me ha trasladado a mí con representación en esta cámara en estos seis puntos se recogen las ideas que plasmábamos todos en los textos originales y yo creo que es un buen acuerdo que nos podemos dar todos por satisfechos

y en el que obviamente se le ponen deberes concretos a este departamento y que también estaremos por otra parte vigilantes

si se cumplen pedimos que se realice un diagnóstico por parte del servicio corporativo de prevención que identifique y analice las situaciones de violencia creadas y sufridas en osakidetza englobado

antes de finalizar este año una vez que se realice este diagnóstico reforzar las medidas de carácter urgente previa información

que se presente también un paquete de medidas que se someterá a la consideración de los representantes de los trabajadores para valorar de forma conjunta y acordada a aquellas que se puedan implantar y proponer en la primera reunión del comité de prevención corporativo la constitución de un foro para el estudio de las agresiones en el ámbito sanitario impulsar programas de sensibilización y comunicación que potencien una adecuada relación entre profesionales y pacientes

en la comisión de sanidad de todos los avances y todas las actuaciones que se vayan produciendo en los distintos puntos a los que he hecho referencia por lo tanto la disposición de los grupos a firmar este acuerdo yo creo que es un acuerdo positivo que los colectivos

que este parlamento ha estado a la altura de las circunstancias y ahora también esperar que el ejecutivo ponga en marcha y que los deberes que le hemos puesto los veamos más pronto

honekin amaitzeko neurri integralak eta eraginkorrak beharrezkoak dira tenemos que encontrar la manera de terminar con las agresiones

sean accidentes o incidentes sean agresiones físicas verbales psicológicas cuatro o cuatrocientos porque un hecho aislado de estas características ya es en sí un problema

en las causas por qué se producen estas agresiones y sobre todo qué se podría haber hecho

porque si bien es cierto que la mayoría de ellas se producen en el servicio de urgencias influenciadas a veces por situaciones de estrés o por la incertidumbre de familiares

y muchas otras tienen que ver con enfermos o enfermas mentales no podemos bajar la guardia porque nos podemos encontrar con casos como estos en cualquier lugar y en cualquier momento y tampoco podemos perder de vista los recortes

el colapso de los servicios de urgencias por poner un ejemplo saturación que inquieta a las personas que esperan a ser atendidas y por otra parte también deshumanizan el servicio vasco de salud

para analizar en profundidad esos episodios violentos un diagnóstico que no se quede en ese cuestionario entre profesionales un diagnóstico que ayuda a tomar medidas correctoras para terminar con estas situaciones de violencia para identificar las causas en profundidad porque solo así conseguiremos evitar que vuelvan a ocurrir y ese es uno de los puntos que incluimos en esta enmienda de transacción esas medidas se tendrán que analizar y consensuar también con los trabajadores

estas agresiones pedimos poner en marcha ese foro que existe pero que no se reúne porque creemos que es el lugar indicado para compartir impresiones

es importante impulsar programas de sensibilización para evitar estas situaciones de violencia que ayuden a potenciar la convivencia y la buena relación entre profesionales y pacientes porque desde hace diez años siguen existiendo los mismos carteles la misma campaña informativa y evidentemente y también la laboral ha cambiado durante todos estos años

sensibilización también tienen que adaptarse a la realidad actual todas estas medidas se implantarán en un espacio de tiempo relativamente corto y por supuesto el departamento de salud tendrá que comparecer en la comisión de salud para informar sobre todos estos

como habrán comprobado entre las dos personas ya que hemos intervenido existe coincidencia de argumentos horregatik lortu dugu akordioa uste dugu akordio

señorías hoy nos reunimos para buscar para fijar y acordar una posición atendiendo un problema expresado por los profesionales del servicio vasco de salud un problema que los socialistas trajimos a la agenda de este parlamento

sindicato que representa a profesionales de la enfermería una vez escuchada la descripción de los servicios existentes para prevención y tratamiento de las agresiones

es decir después de haber escuchado a ambas partes corresponde actuar pero no nos corresponde al parlamento proponer medidas concretas detalles

en el voluntarismo y sobre todo estaríamos dejando al margen a los propios profesionales por otro lado creo que la señora garrido se precipitó en la presentación de la moción como si en este parlamento nos dedicáramos a hacer carreras para ver quién se ocupa en primer lugar de atender a un colectivo aquí

para que cada grupo en función de sus capacidades sensibilidades y posibilidades traslademos a esta cámara una posición por cierto cuanto más apoyada mejor ara mover al departamento de salud actual para ello los miembros del satse y el departamento

ofrecieron un plan abierto de actuación y explicaron también

y que los propios profesionales de enfermería nos trasladaron y priorizaron como puesta en marcha que eran protocolos de actuación y de prevención bien ahora desde este parlamento pongamos plazos ponemos plazos

proponer medidas y acordarlas con quienes tienen el riesgo de sufrir las agresiones y en un plazo concreto en este caso final de dos mil catorce y después de ello después de que los responsables y los profesionales determinen cómo prevenir cómo mediar cómo proteger al agredido será el momento de que esta cámara conozca los resultados

lo que haya que hacer pasará previsiblemente por revisar servicios ya existentes pero que no resuelven el problema con suficiencia como pueden ser la asistencia psicológica y jurídica que ya existe pero que mejora como existen los servicios de seguridad en los centros sanitarios pero se ha demostrado que no son suficientes la propuesta original

todas las preocupaciones que nos trasladaron los profesionales y en este caso aludimos a un ámbito nuevo tome nota el gobierno que cada vez tiene mayor

además de las atenciones de urgencias ya fuera del centro de salud que no se contemplan lógicamente en detalle en la propuesta en la pasada legislatura

la necesidad de atender a los pacientes crónicos en el domicilio cada vez esta sociedad envejecida tiene mayor número de pacientes crónicos y por tanto cada vez más nuestra sanidad nuestros servicios sanitarios van a atender en el domicilio

una manera muy eficaz muy eficiente también para el servicio sanitario y muy satisfactoria para los pacientes

por eso estas medidas de seguridad creemos que aunque no se explicitan el gobierno debe tomar nota para hacer hincapié en este ámbito

también creemos que será necesaria la implicación de los servicios sociales porque cada vez más el ámbito social va a colaborar con los servicios sanitarios

socio sanitaria por tanto estas medidas que se propongan de protección a los profesionales deberán contemplar también

de los trabajadores del ámbito social que están colaborando con los profesionales sanitarios y hoy en este parlamento recogemos todas estas preocupaciones

a establecer un plan de actuación efectivo

con quienes mayor conocimiento tienen con los datos con la experiencia y todos ellos pueden definir la garantía de la prestación de un servicio

a los ciudadanos pero también con la mayor seguridad posible para estos profesionales que lo desempeñan finalmente yo también quisiera agradecer la voluntad de acuerdo

de esta cámara para conseguir un acuerdo que atienda a las necesidades planteadas por los profesionales e impulse la actuación del gobierno para resolver estos problemas

nada nuevo y tampoco creo que vaya a decir nada diferente de lo que ya se ha dicho en este debate sí quiero en primer lugar condenar

a estos profesionales y en general a todos los empleados públicos en segundo lugar quiero también mostrar el apoyo al gobierno vasco en lo que se refiere a las medidas óptimas que vaya a tomar o que vaya tomando o que haya empezado a tomar ya en estos últimos meses

creo que en este asunto como en algunos otros debemos intentar ir de la mano lo cierto es que de momento las medidas implementadas

no al menos todas ellas o no están siendo suficientes es un problema que viene de atrás que no es nuevo en los últimos meses hemos podido asistir a distintas comparecencias a la comparecencia de satse planteada por el grupo socialista también escuchamos la interpelación realizada

popular que en fin como consecuencia de la cual trae esta moción también la comparecencia del consejero todos hemos escuchado la reivindicaciones de unos y los argumentos de todos

es un problema que se ha ido agravando con el paso de los años las agresiones van en aumento más allá de que las agresiones hayan disminuido

concluir que más bien van en aumento o al menos desde luego no se reducen y por lo tanto no podemos estar

se necesitan nuevas medidas entre todos y para eso hay que intentar apoyar también en esto al gobierno para que se pueda resolver este grave asunto en el año dos mil trece según satse se produjeron cuatrocientos trece episodios violentos siendo los más perjudicados los enfermeros y las enfermeras y en general los trabajadores de están de cara al público aquellos que están cercanos a los pacientes

tremendos solo se denuncian un once por ciento de las agresiones sufridas ocho de cada diez enfermeras han sufrido en algún momento una agresión verbal o física y además satse señala acertadamente que las cifras de osakidetza no muestran todas las agresiones porque muchas ni se registran

ni se denuncian a partir de todas estas comparecencias de todo lo que hemos podido leer escuchar nosotros realizamos una enmienda

ha sido básicamente incluida en esta enmienda transaccional que ustedes han firmado si acaso hay que decir que no se ha incluido lo que venía a ser el punto número tres de nuestra enmienda de totalidad que creo que también es un asunto importante cuando hacemos referencia a los recortes que ha habido y que ha impulsado este gobierno nosotros proponíamos

satse lo señala también como causa del incremento de las agresiones acabar con los recortes con la precariedad

ya que los mismos contribuyen a crear un clima de malestar en los usuarios que también propicia

a los empleados de la sanidad pública vasca no sé ha incluido finalmente pero en todo caso votaremos a favor de la transaccional creo que hay que apoyar al personal sanitario creo que hay que incidir en la educación en la educación de la ciudadanía como en tantos otros temas este también aquí es fundamental

es fundamental también y así lo explicó satse que los ciudadanos conozcan exactamente cuáles son sus derechos es fundamental trabajar

acabar con los recortes con la precariedad laboral y con la saturación de los centros en fin otras muchas cosas ya se han dicho y están también incluidas en esa

solicitaba que fuera considerado un delito contra la autoridad pública este tipo de agresiones

más información más comunicación y más educación en general yo creo que estamos todos básicamente de acuerdo la transaccional recoge muchas ideas y muchas medidas

aunque también creo que andamos tarde con este grave problema en todo caso votaremos a favor de la transaccional eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

egun on denoi sailburuak antes de entrar

sí me gustaría realizar una pequeña reflexión estas semanas

una sensación que me ha recordado a un caleidoscopio que tenía de crío me encantaba aquella máquina

si la tratabas sin cuidado atropelladamente precipitadamente

en este sentido qué diferente es debatir decidir cuando se tiene una imagen global nítida

definida en una cuestión a diferencia o que cuando se tiene una imagen parcial desenfocada distorsionada

y en consecuencia qué diferentes son los resultados finales centrándonos en el punto de hoy

una preocupación que compartimos todos muestra también es el texto que hemos transado sí quería destacar de forma previa

médicos enfermería auxiliares celadores personal administrativo realizan a diario destacar especialmente la dificultad

que en ocasiones límites y de gran tensión enfrentándose a la enfermedad al dolor a la pérdida de la salud

en salud mental en unidades de cuidados intensivos y también incluso situaciones en atención primaria creo que también tenemos que destacar sin duda

el respeto y el amable trato que habitualmente dispensan a nuestros profesionales sanitarios me gustaría dejar claro que las agresiones son sin duda excepciones aún así nos preocupa mucho a nuestro grupo parlamentario

sin duda nos preocupa mucho a todos sí quería dar unos datos numéricos porque aquí hemos visto algunas fotos

que son públicos fueron recordados por el consejero

tres agresiones sin duda son muchísimas en el año dos mil trece

en una foto un poco más amplia dieciseis millónes de consultas

un millón quinientos mil estancias diarias hospitalarias sin duda son unos datos

tener una agresión ya es mucho debo subrayar la preocupación y la ocupación en este asunto ocupación se hablaba aquí de mover

se está actuando sin duda esto no es algo nuevo lo recordaba también el consejero como ya

en el año dos mil tres hace once años no hace unos meses hace once años

en una organización pionera en el abordaje de situaciones violentas contra sus profesionales con la puesta en marcha del primer protocolo de actuación y desde entonces ha seguido avanzando sin duda me gustaría destacar también las aportaciones a esta imagen a la globalidad de esta imagen del director de recursos humanos de osakidetza en su comparecencia de en comisión de salud del pasado dieciséis de abril

en su presentación hacía

y participativo el objetivo es la gestión de todo lo que tenga que ver con las agresiones en el marco de la prevención de riesgos laborales persiguiendo sin duda reducir drásticamente estas situaciones

nuestro objetivo es tender a cero para ello para conseguir estos objetivos

estas claves a mí juicio unidas a otra información que tenemos antes de interpretación dan esa imagen nítida y global son claves que no teníamos por la precipitación en la presentación de esta iniciativa como algún otro portavoz también lo ha recordado las claves

mejorar las condiciones laborales la salud y la seguridad laboral

existencia de protocolo específico de actuación violencia en el trabajo

garantía desde osakidetza de asesoramiento y asistencia jurídica a los profesionales

investigación de todas las agresiones declaradas registro que incluye tanto accidentes se nos comentaba también anteriormente agresiones que producen lesión como incidentes agresiones que no producen tal lesión un hito

la publicación del decálogo declaración de principios contra las agresiones

y se sigue haciendo en esta misma línea se mueve el acuerdo parlamentario de hoy este acuerdo es una continuidad de lo realizado hasta hoy un rápido análisis para no alargarme mucho

un proceso continuo de diagnóstico hasta ahora también se han realizado esos diagnósticos lógicamente medidas medidas adecuadas consenso con los trabajadores en el párrafo tercero foro de observación campaña de sensibilización o campañas de sensibilización y dar cuenta al parlamento en definitiva y como

de salud desde siempre y en este sentido ese es el objetivo proteger a nuestros profesionales sanitarios que significa proteger nuestro sistema de salud
público universal y de calidad y que supone en definitiva proteger a nuestra ciudadanía eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

muchas gracias presidenta lo cierto es que el lehendakari

cuatro meses dijo que el gobierno vasco iba a aportar diez millónes de euros que entregaría al ayuntamiento de

para la remodelación de un campo de fútbol en concreto para la remodelación del campo de anoeta de la real sociedad nosotros observamos las declaraciones del lehendakari observamos sus argumentos

de euros de dinero público para la remodelación de un campo de fútbol en una época de crisis económica y de recortes sociales

el lehendakari justificaba esta aportación este compromiso de aportar esos diez millónes de euros diciendo que esa decisión se tomó después de haber analizado los flujos económicos que supone una inversión de esta naturaleza

y había analizado de manera seria y rigurosa cuáles iban a ser los flujos económicos y financieros que aportaría esa financiación esa ayuda de diez millónes de euros lo cierto es que el lehendakari se comprometía a aportar esos diez millónes de euros y hablaba de

los mismos para el año dos mil dieciséis y los mismos para el año

y añadía que participamos en anoeta como lo hemos hecho en san mamés

buesa arena pero lo cierto es que el lehendakari decía que se había hecho un estudio que habían analizado esos flujos económicos y financieros

dijimos bien vamos a pedir al gobierno estos estudios este análisis que realmente parece ser que habían hecho y lo cierto y cuál es nuestra sorpresa que el gobierno

un estudio realizado por la propia real sociedad y la verdad es que visto este estudio

por la real sociedad no sé si alguno de ustedes lo han estudiado la conclusión evidente es que esto no es un estudio sino que viene a ser una especie de cuento de la lechera se habla del posible incremento de ingresos televisivos

este asunto con la remodelación que se propone se realizan en ese estudio cálculos absolutamente ficticios se habla de que la real sociedad supone

a través de cálculos tramposos cuando todo el mundo sabe que no es así basta con leer el estudio yo le ánimo

es muy sencillo no se introducen determinados gastos como puede ser la seguridad pública el transporte y finalmente y según su resumen este estudio concluye que la remodelación de anoeta supondría supone casi trece millónes de nuevos ingresos y solo seis coma cuatro millónes de nuevos gastos es decir que incluso la real sociedad obtendría unos beneficios anuales de seis coma cinco millónes de euros como consecuencia

que en parte financia el gobierno vasco o pretende financiar y la conclusión de todo ello evidente y sencilla por otro lado es decir que se lo paguen ellos si como consecuencia de esta aportación van a tener un beneficio

que se lo paguen ellos nosotros queríamos un estudio queríamos un estudio que justificará pero lo cierto es que no lo ha habido se propone el pago de diez millónes de euros sin haber realizado un estudio económico financiero sobre el coste real de las obras y sus efectos ni de un plan de viabilidad

no lo justifica y este estudio de la real sociedad ni siquiera se puede calificar como estudio es un cuento chino está todo básicamente falseado

y muy poco responsable que el gobierno nos entregue un estudio

para justificar una aportación de diez millónes de euros escuchamos los poderosos argumentos del director de deportes del gobierno vasco para justificar esta aportación

diciendo que es un equipo que todos los guipuzcoanos tenemos en el corazón o que se diga que en el pasado hubo otro tipo de aportaciones de fondos públicos para determinados deportes profesionales vamos a ver yo no digo que la real sociedad no traiga beneficios económicos a la ciudad de san sebastián evidentemente

pero lo menos que se puede exigir es que si el gobierno vasco aporta dinero público para el deporte profesional

ha analizado los flujos económicos de determinada operación lo explique y es lo que nosotros sencillamente pedimos evidentemente ha habido más casos

de las aportaciones públicas a san mames esto no es una cuestión de luchas territoriales no es una cuestión de

de rigor de seriedad en el uso del dinero público

y de ahí nuestra proposición no de ley y exactamente

por un lado pedimos queremos pedir al gobierno vasco que justifique la aportación de diez millónes de euros a la real sociedad para la remodelación del estadio de anoeta

y que sea presentado durante el actual periodo de sesiones en el parlamento vasco donde sería analizado por los grupos parlamentarios para su aprobación o rechazo y por otro lado instar al gobierno a que justifique de manera seria y creíble y con estudios económicos

cualquier proyecto de inversión pública relevante y en concreto cualquier tipo de aportación económica relevante en infraestructuras deportivas

remodelación ha sido después modificado como consecuencia de un recurso lo cierto es que

la modificación del plan urbanístico se echó para atrás y a partir de ahí se presenta un nuevo proyecto y el gobierno vasco insiste en que igualmente aportará esos diez millónes de euros nosotros lo que proponemos en definitiva es seriedad que si se va a hacer una aportación se explique por qué y para qué qué beneficio supone o supondría para los ciudadanos y que pase por este parlamento

y brevemente voy a intervenir no para defender la real sociedad señor maneiro porque no la tengo en el corazón a decirlo así

si a alguno tendría que venir a defender o a decir vendría a dar la enhorabuena al eibar que ha subido a primera

es a la ciudad de san sebastián porque yo creo que usted ha generado aquí un debate de forma equivocadamente

usted en cada momento está hablando y en su pnl habla que la real sociedad es la que va a percibir

en su proposición no de ley dice que es la parte interesada para recibir las ayudas y las ayudas no las va a recibir la real

porque el estadio de anoeta es un estadio público municipal y no pertenece a la real sociedad por lo tanto ella no va a ser la beneficiada la beneficiada va a ser

y todos los guipuzcoanos también habla usted

o los catorce del buesa pero hay que decir que en ninguno de los dos casos el dinero lo percibió el club

en la cual el gobierno vasco tiene un veintidós por ciento de porcentaje la diputación otro veintidós por ciento otro la bbk y otro el athletic y un ocho el ayuntamiento de bilbao y en el caso del buesa arena se hace

con el estadio de anoeta la subvención

al ayuntamiento de donosti san sebastián y luego posteriormente será el ayuntamiento el que deba de hacer esa aportación

como la real sociedad para realizar la remodelación

del estadio de anoeta pero lo que tenemos claro es que la remodelación

de todas las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento de san sebastián y usted parece que como no tiene representación en el ayuntamiento viene aquí

pero le voy a decir que si usted habla de seriedad a la hora de plantear inversiones usted ha nombrado aquí la inversión de san mamés y del buesa

ninguna proposición no de ley para ir en contra de ellas entonces me parece a mí que

mejorará sus servicios va a generar trabajo generará el tejido empresarial comercial y hostelero de la ciudad

mayor número de personas que vengan turistas a la ciudad guipuzcoana en definitiva como ha dicho el gobierno y en eso estamos con ellos

económica de la capital guipuzcoana y no quiero entrar porque no

y luego que el estudio que se tenía era el que había hecho la real sociedad las formas que ha tenido el gobierno puedo compartirlas con usted pero lo que no voy a compartir con usted es lo que usted plantea

con un estudio económico financiero no lo vamos a compartirpor parte del partido socialista porque eso es el modelo de gestión que tiene la derecha el modelo de gasto ingreso

económico y nosotros no planteamos así desde la izquierda desde el partido socialista sino que tenemos que mirar que

de los donostiarras y de todos los guipuzcoanos por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad

a continuar apoyando la remodelación del estadio público de anoeta y a realizar la aportación al ayuntamiento de san sebastián

lo que pasa que nos sorprende que eh bildu que es el que ostenta la alcaldía en el ayuntamiento de san sebastian no haya presentado ninguna enmienda a la totalidad en contra de su propuesta y también nos sorprende que

por responsabilidad y con coherencia con lo que decidieron en el ayuntamiento de san sebastián hoy

guztioi buenos días a todos señorías ya se han dado datos por lo tanto yo tampoco me detendré en ellos para no aburrirles y sobre todo para no reiterarme pero sí compartir un dato general

centrar el debate y es que es el ayuntamiento de san sebastián

el que anuncia la convocatoria de un concurso público para proceder

del estadio de anoeta se han producido varias reuniones intensas reuniones desde hace mucho tiempo esto no es nuevo esto viene siendo un debate y

como ustedes bien saben son compartidas por el partido popular les decía que han sido muchas las reuniones de trabajo muchas las reuniones también entre técnicos

con la real sociedad con diversos partidos políticos al menos con nosotros

resultante de eso de estas conversaciones el lehendakari anuncia recientemente su decisión política la decisión política de este gobierno para colaborar en la reforma del estadio de anoeta

entiendo de diez millónes de euros comenzando en el año dos mil quince

político estamos ante un anuncio que se tendrá que concretar en los presupuestos generales de la comunidad autónoma que suponemos como es ordinario el gobierno vasco presentará en esta cámara y es el momento en el que tendremos la oportunidad de discutir de debatir

gobierno vasco y de conocer otras circunstancias también que ayuden a profundizar en su justificación técnica

en su idoneidad política nosotros les anunciamos desde ya que el gobierno vasco contará con nuestro respaldo

que contará con nuestro respaldo el ayuntamiento de san sebastián también para impulsar este proyecto que modernice que renueve que dote de una nueva infraestructura interesantísima no solo para la real sociedad obviamente que sí sino también para la ciudad de san sebastián

de euskadi y sostenemos esta posición porque es importante también sostener y argumentar las posiciones

el primero de ellos es el retorno económico que una inversión de estas características va a tener obviamente para el

pero va a tener para la ciudad de san sebastián y para la hacienda pública

en segundo lugar por el retorno social y retorno deportivo que entendemos que una modernización y que una reforma del estadio de estas características también va a provocar

me interesa mucho resaltar y que probablemente a mucho de ustedes no les interese

se dote también de una nueva referencia arquitectónica

y son inversiones interesantes y también de una nueva referencia de esparcimiento para la ciudad para la ciudadanía y para la ciudad

porque moderniza las instalaciones de uno de nuestros clubes de primera división y supone un impulso objetivo también para la real sociedad convirtiendo el estadio y ese debería de ser un objetivo irrenunciable

de ser un espacio de equipamiento deportivo

por el control público de la inversión que se va

como no podía ser de otra manera pero como parece que alguien tiene la tentación de utilizar el argumento en contra yo creo que es importante que lo mantengamos

un concurso público convocado por una institución pública convocado en este caso por anoeta kiroldegia por el ayuntamiento de san sebastián y la real ha anunciado ya que se va a presentar a ese concurso público con una propuesta

asciende a esa cifra de los cuarenta millónes de euros que ya han anunciado también que cuya intención es incluso

de esos cuarenta millónes han anunciado también que treinta y esto es muy razonable

y el restante sería asumido en este caso

la subvención directa que el gobierno vasco hace a anoeta

por lo tanto hay un control público en el ayuntamiento de san sebastián

de la ejecución de este concurso de su adjudicación y del desarrollo del proyecto en el ayuntamiento de san sebastián

convocar el concurso y garantizar su ejecución ajustada derecho como en todas las administraciones

hay un control parlamentario sobre la aportación que ha anunciado el lehendakari que ha anunciado el gobierno vasco que

de los presupuestos como les decía anteriormente del año dos mil quince y siguientes por lo tanto y acabo ya señorías creemos que esta es una oportunidad para la ciudad de san sebastián creemos que nos encontramos

para la real sociedad y creemos que es una oportunidad que ni la real sociedad ni los donostiarras ni los guipuzcoanos debemos de dejar pasar no es una inversión a fondo perdido

sino es una inversión que va a tener retornos para los ciudadanos y esas son las inversiones que cuentan

que a nuestro juicio merecen el respaldo político que es lo que hoy aquí
queremos expresar muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

maneiro jauna usted considera un escándalo que el gobierno no haya realizado un estudio paralelo al presentado por la real sociedad

para desautorizar dicho estudio vale confiarse de personas técnicas que conocen el asunto y que según usted han analizado esta especie de estudio de la real sociedad esto lo dijo usted en este parlamento con motivo de una pregunta realizada al respecto

es decir el análisis de dicho estudio realizado por el gobierno vasco por muy riguroso que este haya sido no sirve

es necesario realizar un proyecto y un estudio económico financiero paralelo sin embargo para desautorizar y denostar el acuerdo es perfectamente válido

que conocen el asunto sin necesidad alguna de un proyecto paralelo y de un estudio económico financiero hombre visto el rigor de este planteamiento y

en papel mojado pero además el planteamiento realizo por el señor maneiro se olvida de una serie de hechos fundamentales

si no estoy mal informado hay un acuerdo unánime del ayuntamiento para realizar dicha remodelación

dice usted que el único estudio que existe es el realizado por la real sociedad

y el ayuntamiento con qué datos tomó el acuerdo no olvidemos que el proyecto es del ayuntamiento y no del gobierno a este respecto en primer lugar también le tengo que decir que no siempre procede realizar un estudio o estudios alternativos si el análisis del presentado lleva a la conclusión de que es suficiente para adoptar una decisión como es el caso que nos ocupa y que al parecer

ha servido para que el ayuntamiento también y al igual que el gobierno

haya tomado el acuerdo de que se necesita realizar la remodelación

una aportación oyéndole a usted parece que todo queda ahí y no es así como usted debe de saber en la fórmula

del mismo y los posibles concesionarios o aportan sus proyectos de modo que la concesión seotorga a quien dentro de la legalidad

cumpla los requisitos establecidos con la administración en sus pliegos pliegos contractuales que entre otros establecen las bases económicas

todo ello dentro de un procedimiento perfectamente tasado y reglado dice que esta infraestructura es socialmente innecesaria que no responde a una necesidad real de los ciudadanos

con claridad dónde están los errores en los distintos niveles de la administración porque el gobierno lo que hace es una aportación a un proyecto acordado y definido por el ayuntamiento por unanimidad

en el que se contextualiza dicha aportación es decir que solo hay un proyecto y que

solo hay un proyecto y que es de parte es no decir nada en cuanto a la viabilidad y a la oportunidad de las decisiones tanto del ayuntamiento como del gobierno tal y como acabo de explicar

de las bases que para la concesión que establece el ayuntamiento

y en base a dichos fundamentos valorar si la aportación del gobierno al proyecto es o no la adecuada aún así le voy a dar unos datos solamente

dejando aparte todo lo que aparezca en los pliegos económico administrativos en este sentido

teniendo solamente en cuenta el efecto directo ha sido noventa y ocho millónes de euros

usted ya dice que no pero lo dice en base a la opinión de ciertas personas expertas que conocen el asunto como ha dicho y no en base a un estudio económico

en dos mil trece dejando de lado el iva de la venta de jugadores ha sido de catorce millónes de euros supongo que esto también con los mismos argumentos dice que no

hay un apoyo unánime el treinta y uno de enero de dos mil trece el ayuntamiento de donostia aprobó con unanimidad insisto con el apoyo de todos los grupos políticos municipales la renovación del estadio de anoeta

emakumezko taldearentzat estos son datos que están contrastados y no por los amigos que usted conoce por muy expertos que digan que sean la actuación del gobierno

por lo tanto le reitero mi petición en el sentido de que nos explique los errores del proyecto detallando los distintos niveles de decisión y en qué y estudio económico financiero basa sus datos para rebatir los datos de los pliegos contractuales que usted debe de conocer bien para traer esta proposición como la ha traído

sin que anoeta kiroldegia cuente con los diez millónes de aportación del gobierno porque renuncian a ellos con el riesgo

alguna otra fórmula cuál creo lógico pensar que cuando un ayuntamiento acuerda por unanimidad aprobar no solo un proyecto de remodelación si no vinculado

creo cabe pensar digo que dicho proyecto se considera estratégico para la ciudad

para posibilitar la remodelación por considerarla estratégica y sin embargo se plantee rechazar la aportación del gobierno aún a riesgo de que dicho proyecto no pueda llevarse a cabo por motivos económicos desconocen ustedes acaso que los proyectos estratégicos generan esa riqueza que hay que distribuir y que

de la cuestión en la que estamos hoy usted nos ha dado una homilía sobre su distribución eskerrik asko eskerrik asko

en lo que se refiere a lo jurídico tengo que decir que no sé qué es exactamente lo que va a ocurrir en el futuro es decir no sé cuáles van a ser los resultados jurídicos y prácticos

del tribunal de justicia del país vasco que tumba el proyecto original

veremos a ver si se va a poder llevar adelante este proyecto lo veremos en los próximos meses en todo caso ya digo que lo importante es lo político

defiende la ciudad de san sebastián yo defiendo los intereses del conjunto de los ciudadanos

que no es la beneficiada la real sociedad sino el ayuntamiento

hay o va a haber o quiere el gobierno vasco que haya una aportación de diez millónes de euros para la remodelación de un campo de fútbol sí o no sí

existe ese compromiso y es lo que nosotros criticamos se dice ha habido unanimidad en el ayuntamiento de san sebastián y usted viene aquí a torpedear esta unanimidad no vengo a defender una idea que considero que es justa y a defender los intereses del conjunto de los ciudadanos

sabrá por qué apoya esto y tendrá que explicarlo es responsabilidad de ellos

y san mamés barria nosotros lo hemos criticado lo hemos criticado todos estos años hicimos una interpelación

y en los presupuestos hemos presentado siempre enmiendas para eliminar esas partidas porque nos parece que efectivamente no es prioritario dedicar

asuntos tal como está el panorama y como está la situación de la ciudadanía hemos criticado todo eso y ahora toca efectivamente el asunto de la remodelación

hablan el señor sémper el señor arieta de dinamización económica de beneficios económicos de lo bueno que será para la ciudad dónde están los datos

un informe riguroso y serio que se nos presente ese informe se analice y veamos si efectivamente salen o no los números eso es lo que estamos pidiendo pedimos ese estudio que supuestamente había hecho el gobierno y resulta que se nos trae un estudio realizado por la propia real sociedad

infraestructura interesantísima retorno económico dónde están los datos dónde están los datos señor arieta ha leído usted el estudio

en la materia para saber perfectamente que es un cuento chino que están todos los datos falseados pregúntele a la señora consejera lo sabe perfectamente esto es una decisión política que se toma para hacer populismo en un asunto que está relacionado con el fútbol y que puede mover

al gobierno le importaba un bledo el estudio que pudiera presentar

y nadie se atreve a criticar estos asuntos nosotros criticamos el buesa arena aquí criticamos el asunto de la remodelación

y donde haga falta y en bilbao la aportación de dinero público a san mamés barria no tenemos ningún problema nos parece un absoluto disparate que en plena crisis económica tal como está el asunto

los datos que justifiquen que el gobierno no tiene que realizar esa aportación hombre yo pensaba que era al revés el gobierno quien justifique esa aportación de diez millónes de euros que pagamos todos tendrá que ser el gobierno esto no es un estudio riguroso esto no es un estudio serio esto no es nada y ustedes lo saben señor arieta y lo sabe la consejera

se toma una decisión política para hacer populismo este es el asunto independientemente de cualquier estudio que se haya presentado que no es tal ya lo digo el tema es en fin no meterse con este asunto del deporte profesional y del fútbol

ese es el planteamiento que ustedes realizan y de ahí nuestra iniciativa en definitiva hay que acabar con las jugosas subvenciones y ayudas al deporte profesional hay que acabar con que los deportistas profesionales reciban un tratamiento fiscal privilegiado como ha venido ocurriendo

financiación pública hay que acabar con las recalificaciones de terrenos como ha venido ocurriendo

o con los avales de deudas incobrables de la comunidad de valencia una absoluta vergüenza en esta época de crisis siempre pero especialmente ahora

seriedad en el uso del dinero público y esto vale para anoeta para buesa arena para san mames y para cualquier otro asunto que esté relacionado con el deporte profesional

ya digo puro populismo pan

se está cansando de que ustedes vengan aquí a derrochar el dinero de los ciudadanos la ciudadanía está harta de estas decisiones cada vez hay más ciudadanos que se oponen
a estas decisiones tal como está el panorama de recortes sociales maneiro jauna amaitzen joan de

de reducciones en la educación pública de reducciones en la sanidad pública todo esto en contra de la mayoría de los ciudadanos

para defender el deporte profesional sin estudios rigurosos ni serios puro populismo y una vergüenza eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta señor maneiro usted dice que usted aquí presenta una idea que es justa para usted

que la idea que presentamos el resto de los partidos también será justa para nosotros y para las personas que han confiado

yo también defiendo una propuesta pensando en las personas porque pensar en la ciudad de san sebastián es pensar en los donostiarras y pensar en los guipuzcoanos

no es pensar en las personas porque la ciudad no son edificios

y usted habla de los datos insistentemente a la consejera la pobre insistiéndole los datos los datos que están le vuelvo a decir

aplica la derecha y no va a contar con nosotros con el partido socialista no es un modelo de mirar el ingreso y el gasto y para ver el beneficio simplemente pero no el beneficio de las personas como usted está diciendo el beneficio económico y si lo hay usted es partidario de decidir hacer la inversión y si no lo hay pues que no se haga no para el partido

el mirar el beneficio de las personas y señora

la afirmación que usted ha dicho hoy aquí no puedo estar en contra de lo que

no se realicen con dinero público yo lo respeto usted lo plantea que la situación de crisis que vivimos no lo podemos permitir

explíquenoslo qué ha hecho bildu en el ayuntamiento de san sebastián

con dinero público qué gestiones ha hecho para obtener dinero de empresas privadas para su financiación díganoslo porque ustedes hanvotado a favor de una remodelación del estadio de anoeta pero luego

a ese problema digan cómo lo van a hacer por favor

prioridades de las personas y considero y el partido socialista considera que la remodelación también es pensar en las personas porque la construcción va a generar empleo

porque va a generar que los bares restaurantes hoteles de nuestra capital mejoren porque también las tiendas de san sebastián por lo tanto

económica y está equivocada usted dice nosotros también estamos a favor de la real si es que en este momento no es que hay que estar a favor de la real o no a favor de la real

es estar a favor de los ciudadanos de donostia san sebastián y señor arieta araunabeña permítame que le pregunte comparto

porque no ha dicho si está a favor o en contra de la proposición no de ley del partido socialista

y si está en contra por favor explíquenos por qué va a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el partido socialista porque no se fía del ayuntamiento de san sebastián porque no se fía de bildu en el ayuntamiento a quién van a dar ustedes la subvención si no se la dan al ayuntamiento de san sebastián es que

porque la subvención de los diez millónes es una subvención finalista

en otro objetivo el gobierno vasco puede reclamarle esos diez millónes porque no lo ha utilizado con los fines determinados por lo tanto no sé qué problema hay a quién se lo quieren dar a anoeta kiroldegia una fundación que también es del ayuntamiento de san sebastián

que yo comparto que también la tendría viendo la gestión que están haciendo pero no queda otra solución si queremos subvencionar la remodelación por parte del gobierno vasco

gracias señora presidenta muy brevemente han salido muchas cosas en esta tribuna y quizás hay una que

la que me gustaría centrarme es esto de que como estamos en crisis

inversión de ningún tipo porque hay otras prioridades y es cierto que las prioridades son muchas en un momento de crisis económica

cómo contribuir desde los poderes públicos para reactivar la economía que es uno

y nosotros creemos que evidentemente algunas de las cuestiones que aquí se han planteado son fundamentales para salir de la crisis claro que si cambiar el modelo productivo también

defender ayudar a aquellos que peor lo están pasado

también los poderes públicos pueden destinar diez millónes de euros en tres años el gobierno vasco en los presupuestos de la comunidad autónoma vasca

diez millónes de euros en tres años si considera que esa subvención ayudar a la reactivación económica de nada más y nada menos que de la capital de un territorio histórico de su comunidad autónoma

porque usted tiene tendencia a tachar de populismo todo aquello que no comparte y no es el caso creame hay opiniones diferentes a la suya que pueden estar sustentadas también en criterios objetivos y razonables

quizás si busca y rasca aquí encuentra a alguien más razonable al que no le mueve el populismo quien

hablando de populismo porque además luego deriva su intervención sobre la fiscalidad que soportan los jugadores de primera división

habla de recalificaciones urbanísticas de avales bueno estamos hablando de un proyecto de remodelación de un campo público

ese estadio de fútbol del que no se va a beneficiar nadie por ninguna plusvalía

terrible constructor no hay ningún lobby extraño que lo que pretenda es obtener alguna rentabilidad espúrea

es un dinero que se va a destinar a reformar y a modernizar una infraestructura pública para dotar en este caso es verdad a la real sociedad de un estadio

de una infraestructura que va a tener un retorno económico sobre la ciudad y sobre el territorio y si otros en otros momentos de crisis económica se hubieran quedado cruzados de brazos

y no aportar algo para salir de esa crisis económicas hoy no tendríamos por ejemplo el guggenheim bilbao no lo tendríamos

pero en un momento determinado de profunda crisis económica las instituciones públicas decidieron apostar por una infraestructura

hay quien decía que en un momento de crisis económica no había que hacer ese tipo de inversiones

y upyd hay quien decía eso pero afortunadamente hubo gente que fue capaz de ver un poco más allá

modernización y su reforma poco tiene que ver en cuanto a dimensión obviamente con el guggenheim bilbao pero sí tiene que ver algo con la filosofía y la manera de entender también el impulso en un momento como el actual para salir económica y a pesar de que haya quienes solo ven

o solo ven un futuro negro hay quienes creemos que ese futuro dependerá de lo que acertemos o no en las decisiones que tomemos ahora y nosotros creemos que el esfuerzo presupuestario concretado en diez millónes de euros con carácter plurianual

en el conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma desde luego es un esfuerzo que bien merece la pena una infraestructura como es esta por los retornos económicos sociales y deportivos que mal que les pese a algunos va a tener

sobre el apoyo decidido que eh bildu otorga a este proyecto en la ciudad de san sebastián donde gobierna y su actitud hoy aquí pues cada uno que sea responsable

señor maneiro usted ha denominado a los datos cuento de la lechera y no aporta ningún dato para justificar sus afirmaciones lo de los técnicos fue usted quien lo dijo no he sido yo sino que le he repetido lo que dijo usted y lo dijo para justificar precisamente

en vez de datos hace valoraciones pues mire valoración por valoración según usted

y se meten en un proyecto inviable con una inversión importantísima de treinta millónes el cuento de la lechera que dice usted las entidades de crédito son también tontas

las administraciones que apoyan el proyecto son unos incompetentes si no realizan lo que usted señor maneiro les indica en base a las opiniones de algunos expertos que conocen el asunto pero que no han realizado ni el estudio que pide al gobierno ni conocen los pliegos económico administrativos de la concesión

mire el gobierno lo que hace es una aportación un acuerdo de remodelación de anoeta

tenemos que pensar que el ayuntamiento ha adoptado su decisión después de haber analizado el proyecto con todo tipo de detalle el gobierno visto el acuerdo del ayuntamiento y el proyecto de la real sociedad

adecuado social y económicamente teniendo en cuenta todo ello no parece procedente que el gobierno vasco

ni a las bases de la concesión por no ser ni necesario ni de su competencia cuestión distinta

que lo haya analizado a los efectos de realizar la aportación

el análisis considere justificada la aportación por su interés social y su viabilidad económica no creo que nadie y creo que usted tampoco tal vez sí defienda que el gobierno a la hora de hacer una aportación a todos los proyectos que se presentan por los ayuntamientos tenga que hacer un proyecto

alternativo a cada proyecto municipal sin perjuicio claro del análisis riguroso de los proyectos que se le presentan por las demás instituciones que es la práctica habitual pues en este caso tampoco tiene por qué ser diferente señor maneiro bildu

tópicos aparte sobre el pnv es que oyéndole antes me ha venido a la cabeza lo de mi reino no es de este mundo

y mi reino no es de este mundo porque en cuanto a la generación de riqueza y empleo y a la distribución

creo que no saben cómo se genera por cierto no han sabido explicarlo hasta el momento
al menos creo que están bastante en la higuera pero ese es otro debate isiltasuna mesedez ez du amaituta

decir una cosa en el ayuntamiento de donostia y otra cosa en el parlamento vasco de esa forma de entender la política sinceramente no nos parece precisamente un modelo de transparencia visto que para ustedes un proyecto que

deja de serlo y que el único que ha cambiado es la modificación del plan general que ya no se va a poder realizar creo que debieran de ser valientes y decir que el único que les interesaba era la modificación del plan general de ordenación urbana

y como ha habido una sentencia que lo imposibilita la remodelación de anoeta propuesta por la real sociedad

es curioso que lo que estaban dispuestos a financiar mediante la modificación del planeamiento no lo estén mediante una aportación directa del gobierno

el ayuntamiento no solicita al gobierno que se realicen aportaciones a diversos proyectos y o su financiación

considerado también por ustedes hasta ahora estratégico

me parece sorprendente cuanto menos claro que todo esto es posible si se juega con que el proyecto vaya a salir por el apoyo de otros y que el grupo municipal de bildu

me parece una manipulación política señor zaballos me ha preguntado a ver qué vamos a hacer yo creo que en vista de lo que aquí se ha debatido

al menos nosotros claramente estamos de acuerdo con la aportación del gobierno

esa concesión al ayuntamiento porque puede ser perfectamente también a anoeta kiroldegia y eso podría dar lugar a equívocos

que puede ser relevante el que se le de a uno o a otro por la composición de la sociedad y porque

creo que no debiera ser necesario yo le pediría
que retire su enmienda porque tal y como está no se la podemos votar eskerrik asko arieta araunabeña jauna eztabaida amaitu denez

así de claro la decisión libremente adoptada de una sociedad con sentimiento de nación es soberana decidir es

de la ciudadanía en euskal herria existen proyectos políticos diferentes todos legítimos

diferentes también diferentes opciones de estructuración territorial desde la españa centralizada que ansían algunos pasando por el actual modelo económico o el sistema federal hasta la opción del a euskal herria independiente que abogamos

todos legítimos repito siempre que todos y cada uno de esos proyectos la posibilidad de desarrollarse hasta su totalidad y para ello la ciudadanía a de tener la palabra la decisión tiene que estar en manos de la ciudadanía